una grandísima manifestación de corte racista los meses posteriores

a la situación previa de indignidad en las condiciones de acogida a la parálisis en las reubicaciones la falta de atención los hacinamientos la insalubridad el atasco humano

fascista con evidente impunidad desde las autoridades los ataques a los solicitantes de asilo a las ong después vino

a tiros y a gases lacrimógenos las devoluciones masivas en calientes con la complicidad de la unión europea la suspensión

vulnerando la convención de ginebra y el principio de no devolución y todas las dificultades añadidas por la covid portuak itxita

baita hungrian eta hainbat lekutan ere hasta llegar al infame incendio de moria en septiembre

ha dejado moria en definitiva es la gota que colma un vaso que europa ha ido llenando decisión

durante años podemos decir sin dudar que la política migratoria europea hoy sobre el terreno no es una política alineada con los derechos humanos

seguras y protección a las personas vulnerables ni a cumplir la legislación de salvamento marítimo es todo lo contrario es una política fallida centrada en la disuasión la contención de las personas que huyen en terceros países fortalecimiento de fronteras exteriores detención de personas

una política que ha convertido el mediterráneo en una gran fosa común y los proyectos vitales migratorios en una pesadilla una secuencia perversa

que empieza por iniciativa y patrocinio de la unión europea muy lejos de nuestras fronteras exteriores y viene de lejos a pesar de que se nos intente ocultar

dos mil quince se celebró la primera cumbre de la valeta en noviembre

allí se decidió poner en marcha el fondo fiduciario de emergencia para áfrica

dando dinero a niger chad mali mauritania eritrea toda una franja fondos nutridos

de cooperación al desarrollo irónicamente pero utilizando estos para frenar la llegada de inmigrantes a las cercanías de las fronteras de europa cómo comprando equipos militares equipos de vigilancia construcción de puestos fronterizos creación de centros de internamiento detención de inmigrantes en definitiva

europea allí donde no imperan los derechos humanos barbaridades en la primera de las vallas europeas

los acuerdos con los países limítrofes tienen y han tenido el mismo objetivo

enfocado directamente a la contención de emigrantes por eso hay tres millónes y medio de refugiados en turquía hoy

además instauraba el perverso mecanismo de tercer país seguro por el que se deniegan solicitudes de asilo sistemáticamente

acuerdo con la supuesta guardia costera que es en realidad un grupo paramilitar dinero que financia compra de armamento vigilancia fronteriza centros de detención donde hay de manera contrastada

etcétera hasta tal punto que el acuerdo ha traído una denuncia por crímenes de lesa humanidad en la corte penal internacional o el acuerdo último unión europea marruecos con ciento cuarenta millónes de euros para que mantenga marruecos a raya la emigración subsahariana

y para que acepte devoluciones de refugiados de terceros países

una política de vallas de sucesivas vallas a las que he explicado se les suman las vallas propias de las fronteras del sur de europa con toda una praxis encaminada a la expulsión y después está el tapón de las reubicaciones que no funciona

como grecia gracias al infame reglamento de dublín

a la integración para los que han superado todos los obstáculos anteriores en los que hoy no voy a ahondar pero se ha hablado mucho aquí todo ello en conjunto manda

vengáis no vengáis pero a pesar de ello siguen llegando una de las claves nos la daba

uno de los traductores que ayudan a salvamento marítimo humanitario

que nos decía todo lo que no sea matarnos no nos va a detener porque escapamos de la muerte yo vengo de escapar de las bombas de

y en uno de ellos murieron bastantes por qué pasa esto pues porque el aumento del control

que se escojan las peores condiciones para poder intentarlo se escoge la invisibilidad la noche las brumas

pasto para las mafias y todavía queremos endurecer más la situación

se está negociando ahora vamos a un esquema de endurecimiento

de abandono de facto de la legislación internacional el nuevo pacto migratorio

que ya habían fracasado estrepitosamente y nos vamos a un esquema de solidaridad flexible solidaridad flexible que llaman donde cada país puede escoger

y qué paga pues básicamente paga retornos bien a los países de origen bien a terceros países supuestamente seguros

orientando a negar protección internacional a personas que lo necesitan y busca potenciar el rechazo por provenir de un tercer país seguro

es segura libia para las niñas nigerianas traídas con fines de explotación sexual

y el pacto sigue atribuyendo la responsabilidad principal al primer estado miembro de entrada lo que va a impedir que los países europeos mediterráneos solucionen ninguno de los problemas que tienen hoy y en paralelo a todo esto reforzamos la militarización de la frontera con miles de millónes de euros destinados a y con su objetivo de desplegar diez mil

el resultado de las políticas europeas de inmigración es criminal europan gaur egun esango nuke

hola europa cómo estáis somos seres humanos yo creo que no he sentido más vergüenza en mi vida no quiero entrar en más detalles que hay muchos bakarrik eskatzen dut

eta ekiteko lanari y quería terminar hamar segundu mesedez con una frase que ha dicho recientemente elena maleno una de tantas personas comprometidas a las que tenemos mucho que agradecer que decía con razón

se muere porque hacemos políticas que hacen que se mueran transformemos esas políticas eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

este tema es uno de los más relevantes de nuestro mundo quizá hoy es el día que más me duele la limitación del tiempo y el cordón sanitario al que me someten

vox es racista la desfachatez de aquellos que lo afirman es notable nosotros décimos sí a la inmigración pero a una inmigración acorde a las necesidades

hagamos un análisis fiel noble y objetivo sobre la terrible situación del campamento de moria y los otros que están en grecia los datos que voy a dar a continuación vienen de varias fuentes algunas de los propios refugiados decía un niño nos tratan como a perros prefiero morir decía otra niña de siete años era un campamento

vivir aquí es inhumano la mayoría de las personas setenta por ciento

solo tenemos una comida al día respecto a esta situación

que no nos importa que haya tragedias ponen el carro delante de los bueyes

es el resultado de la política irresponsable de europa y de tantos gobiernos nacionales que dan esperanza a una pobre gente que realmente lo están pasando mal en sus países de origen

a los niños que viven como perros abandonados o lo que es peor a los que mueren en viajes sin destino y díganme qué tenemos para ofrecerles señores de la agenda dos mil treinta nuestro país y el resto de europa se desmoronan ante nuestras manos no hay empleo mucho menos lo generamos y los centros de refugiados lejos de convertirse en lugares de esperanza o inserción en la sociedad

donde los niños pasan a convertirse en verdaderos individuos flotantes obligados a ganarse la vida de cualquier modo

jóvenes que ante una sociedad que no es capaz de insertarles

y esto es lo que no entienden en vox no criminalizamos a nadie criminalizamos sus políticas migratorias irresponsables que dan pie a estas circunstancias

españa no está en la situación de poder acoger a tantas personas españa no puede darles una vida digna una vida mejor y sin embargo ustedes insisten insisten con una política irresponsable de llamamiento que da gasolina a las mafias ilegales que da fuerza a las familias que se lo juegan todo sin saber que es a cambio de nada

pero no continúen engañando ayudemos a los países en su origen y desde allí

el resto son solo políticas que sirven para limpiar su conciencia por haber nacido en la opulencia

seré breve hay un acuerdo alcanzado entre la mayoría de los grupos parlamentarios y

y desde luego nos solidarizamos con las víctimas de aquella situación y de aquellos momentos terribles

también le deseamos al señor otero una pronta recuperación

y bueno y también le agradecemos porque haya traído esta iniciativa

nosotros sí confiamos en la unión europea nosotros sí confiamos en el consejo sí confiamos en lo que el parlamento pueda apoyar decidir debatir sí confiamos en la comisión y en lo que hagan los comisarios y el esfuerzo que están haciendo para

pensando que la actuación en el marco de las políticas de la unión europea es el camino

los problemas que se generan más que los problemas que se generan no son problemas abordar las complicadas situaciones humanas en torno a las migraciones al refugio al asilo de las personas en su objetivo de venir a europa bueno hay

el análisis el trabajo de un nuevo pacto de inmigración y de asilo está trabajándose ha habido debates a través del parlamento europeo la comisión diferentes

la unión europea está haciendo esfuerzos importantes para superar esas deficiencias esas insuficiencias a las que me refería al principio

comisaria de interior ylva johansson lo atestigua el esfuerzo de la misma manera que a españa lo ha hecho a los otros países de la unión europea el esfuerzo se ha identificado que hay un problema y hay que superarlo y nosotros ese es el método o el marco de actuación en el que nos centramos la unión europea

deficiencias en europa preocupa la situación en los distintos estados y regiones europeas como esta pues miran a la unión europea para superar las ineficiencias incumplimientos de reglamentos o acuerdos anteriores

que ha sido fundamentalmente incumplido y no ha servido desde luego para el objetivo y los fines que

seguramente que de concepción y de concepto entendemos en ese marco de actuación

podremos hacer cosas desde los diferentes gobiernos regionales de la unión europea

coordinados desde nuestro análisis y compartidos y ese es el marco de la actuación de la unión europea donde tenemos que trabajar entendemos nosotros

que la situación es grave bueno y efectivamente además es que está en juego para la ciudadanía para muchas organizaciones no solamente

de gobierno o las administraciones sino para muchas otras que trabajan en el campo

los migrantes no está en juego efectivamente la credibilidad de la unión europea también en estas políticas migratorias no y todo ello requiere una acción mejor

que la realizada hasta ahora eso es necesario reconocerlo y yo creo que es se es exigente yo también

declaraciones que he visto de determinados comisarios el comisario de migraciones la comisaria de interior pues yo creo

más eficientes no en relación con esa cuestión y nosotros confiamos en ese esfuerzo confiamos

con los derechos humanos eso para nosotros no está en juego a la unión europea se le critican muchas cosas no es perfecta su actuación pero yo creo que el compromiso de los derechos humanos está en el frontispicio de su declaración política luego efectivamente hay que perfeccionar

política y esa estructura y hacerla de verdad yo creo que la voluntad es esa no bien hemos visto una enmienda de transacción que es

no la compartimos en su totalidad nosotros no compartimos sobre todo el hecho de que tener que engordar más el entramado administrativo de nuestra administración con más direcciones o con más bueno puestos

visto informes de la propia administración la de y actuaciones en relación con los refugiados en relación con el asilo en relación con integrarse en foros de debate sobre estas cosas y de y yo creo que

siempre hablan de eso de nuevos observatorios nuevas direcciones nuevos institutos y esto

lo que tiene que dónde se puede desarrollar esas políticas de colaboración para nosotros y de coordinación con el estado con la unión europea y hacerlo también en nuestro ámbito autonómico

de entender que tenemos un papel activo como sociedad rica con los problemas que podamos tener e implicarnos y en ese sentido

que el parlamento vasco respaldase las medidas adoptadas vuelvo a decir hay medidas que se están poniendo en marcha hay debates en el seno de los órganos

en las instituciones de la unión europea parlamento comisión consejo en relación con las políticas

somos partidarios de la unión política de europa y de sus fórmulas de acción común y de sus métodos y de su organización a veces fallan pero lo que queremos es cada día se perfeccionen ese es nuestro planteamiento también en un tema tan sensible como este
muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

la bienvenida y agradecer su presencia y sobre todo su trabajo a la representación de las ongs que nos acompañan hoy gracias a salvamento marítimo humanitario

humanitario de una tragedia humanitaria aquí aquí mismo en nuestra vieja europa aquí al lado aquí al lado de unas playas fantásticas al lado de esos lugares donde disfrutamos de viajes de placer

una europa en la que a pesar de que casi todos nosotros vivimos como dios y nos preocupamos fundamentalmente de muchas tonterías pasan estas cosas

de toda clase y condición que se marchan de su casa que se marchan de la vida que tenían y no se van porque sí no se van ni por capricho ni porque de repente

y a huir para sobrevivir huyen de la guerra

de la pobreza de la muerte anunciada y desde luego lo que no podemos efectivamente

de seres humanos que buscan lo que nosotros tenemos una vida mejor más próspera no podemos permanecer impasibles ante todas esas personas que se encuentran con una absoluta falta de perspectivas de futuro

y especial y singularmente en un contexto de conflictos bélicos y de violación de derechos humanos

en el que en una situación lamentable se hacinaban ya más de trece mil personas de ellas

ha agravado la insiste ya situación insoportable en la que venían intentando sobrevivir todas las personas refugiadas en ese campo y nos pone nos pone frente al espejo de nuestra propia indignidad porque es una pena pero es así

nada se mueve nada se activa hasta que un televisor nos devuelve la imagen de la vergüenza y eso que algo debiéramos saber debiéramos recordar debiéramos tener memoria no hace muchos años porque todavía hay un montón de personas que lo padecieron que siguen vivas entre nosotros

y tuvimos que huir de lo mismo de lo mismo que huyen ellos hoy tuvimos que huir de la guerra de la persecución de las ejecuciones sumarias del hambre de la desesperación

y nos acogieron señorías nos acogieron y nos procuraron condiciones

y como ellos lo harían si nosotros les diéramos ocasión no desperdiciamos la oportunidad y demostramos que con un poco de solidaridad de apoyo y de acompañamiento podemos reconstruir nuestro futuro y una vida digna señorías la europa de la que hablaba debe reaccionar ante lo que está pasando

y también de orden jurídico de cumplimiento del derecho internacional del cumplimiento del derecho internacional

europa debe diseñar coincido con usted señor barrio en que efectivamente las políticas europeas tienen que ser la base de sustentación en que se mueva este asunto que afecta a todos pero debe diseñar y planificar una política común de asilo e inmigración dirigida a cumplir

en marcha todas las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento lo hemos aprobado en otras instituciones y por tanto insistimos hoy aquí es urgente introducir en la agenda europea los visados humanitarios que permitan un acceso seguro a europa

es necesaria también la apertura de centros de recepción dignos en las áreas limítrofes

y distinguir los criterios y sistemas de distribución de las personas refugiadas entre los países europeos

de corresponsabilidad y solidaridad pero también y como cuestión nuclear es imprescindible que europa reconozca el valor de la diversidad

esta perspectiva la diversidad señorías lo digo siempre sé que soy una pesada pero es enriquecimiento cultural es enriquecimiento social pero sobre todo humano

pensamos más y pensamos mejor y esa herramienta nos hace pensar

que es una herramienta que nos hace más libres pero además es que esa diversidad es el futuro que ya está aquí y además ha venido para quedarse

recordaba el señor otero a finales del pasado mes de enero es decir poco antes de la explosión de la pandemia representantes del intergrupo por la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas tuvimos la oportunidad impagable

y de darnos de bruces con la realidad que se vive en un campo como ese que es muy parecido primo hermano del de moria y les aseguro

imprime carácter y que no es baladí ese adagio que dice y que afirma que una imagen vale

de hecho tienen ustedes en un montón de sitios para poder observar esas fotografías de cómo es

el sitio donde se encuentran todas estas personas y no es difícil imaginar como también decía el señor otero que las condiciones de vida tan duras de hacinamiento y salubridad y miseria

les aseguro que no deja indiferente a nadie yo tampoco he pasado tanta vergüenza en mi vida y la realidad de esos campos que te golpea como un puñetazo en mitad del estómago creo que tiene mucho que ver con que hoy hayamos podido llegar a este acuerdo

tan fácil porque hemos sido testigos in situ de la miseria que pudimos

la actuación que hacen allí muchas organizaciones no gubernamentales con mucho esfuerzo y con muchas trabas y voy a recordar por ejemplo a cruz roja a médicos sin fronteras

para mujeres y madres yo creo que este acuerdo no es fruto de la casualidad es fruto de ver y también del convencimiento creo que íntimo de que toca dejar de mirarnos a nuestro propio ombligo y aunque sea así a fuerza de golpes pues bienvenido sea

en primer lugar en cuanto al grupo tercero

mijangos que no ha podido venir hoy que nos invitó a esa experiencia durísima pero inolvidable del campo

de alguna manera para explorar estas vías de acogida que recogemos en ese punto de acogida en euskadi a personas especialmente vulnerables en lo referente al cuarto solo quiero

señora artolazabal el pasado lunes y tuve ayer el martes no

sobre este tema organizado por el ayuntamiento de vitoria

fuente tuvo presentó explicó y anticipó lo que va a ser la futura dirección de migración y asilo y por último y en lo relativo al quinto punto

que aparece en el quinto punto como digo habrá de desarrollarse

viendo y yo entiendo que este plan lo que va a hacer fundamentalmente es consolidar una estrategia global de acogida desde el principio de colaboración de corresponsabilidad y de solidaridad tal y como además se recoge en el acuerdo de gobierno que firmamos entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista

termino señorías a ver cómo yo creo que esta tragedia nos enfrenta a nosotros mismos

pero de vez en cuando afortunadamente no sé si porque lo decidimos o porque nos vemos obligados a reaccionar lo hacemos y de vez en cuando ponemos un pequeño

de justicia y de ejercicio efectivo de derechos humanos no es suficiente pero de momento con eso me quedo agradezco a todos los

y solicitaría del partido popular del grupo popular que

con lo que él llama con lo que usted llama señor barrio un engrosamiento de la estructura

las fronteras no entienden de dolor hitz hauek oin dala laurogeita hiru urtekoak

paktu soziala en el pacto social para la migración que acabo de mencionar existen tres puntos de partida muy claros el pluralismo como

defendiendo una sociedad compuesta por personas de culturas y procedencias diversas y comprometida con los valores del pluralismo intercultural para construir una ciudadanía inclusiva bigarrenez

ética entendiendo que los nuevos retos migratorios constituyen una interpelación ética que apela a la solidaridad la no discriminación

y autóctona y en tercer lugar la necesidad como premisa pragmática la necesidad de inmigración para responder distintas necesidades valga la redundancia que la sociedad vasca reclama

se introducían también distintas opciones transversales a estos puntos y también ciertos compromisos específicos de los cuales me gustaría extraer especialmente tres

promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen el proyecto migratorio de la persona migrante y la necesidad que en europa plantea el reto demográfico

actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de solicitantes de protección internacional

como en euskadi y ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad con especial atención en mujeres menores y víctimas de violencias de derechos humanos

mediante este acuerdo rechazamos todo tipo de vulneración de derechos humanos pidiendo a su vez a las instituciones europeas que tomen medidas para que se cumpla la legislación internacional sobre asilo

y de un modo sistematizado el deber de solidaridad en base a los valores e ideales europeos en este sentido el marco y objetivo último de esta iniciativa

de la actuación institucional en relación al hecho migratorio es una clave transversal de distribución del compromiso de acogida e integración ante el reto migratorio en sus diferentes manifestaciones una propuesta concreta para ello que incide directamente en lo que hoy nos compete con esta proposición no de ley las personas refugiadas y solicitantes de asilo

encontramos gobiernos paralizados por el temor al populismo racista

artolazabal sailburuak aipatu zeuen moduen en el ámbito de las políticas de migraciones y asilo

debe estar basada en el respeto de los derechos humanos y en el principio de solidaridad

pásese usted por la tarde y le atenderán quien está a la tarde salvamento marítimo humanitario hori da bizi daurien eguneroko errealitatea eta

eta bizitza duin bat lortu arte bereziki sentiberak diren pertsonak babestuz se trata de proteger a todos los refugiados y a todas las refugiadas se trata de personas de mujeres víctimas de violaciones sistemáticas en los campamentos que se les aplica el toque de queda nocturno

de niños y niñas sin futuro de familias destrozadas de vidas truncadas ni qué decir sobre las más de veinte mil personas que han fallecido en aguas mediterráneas

en sus propios países no salvar vidas es inhumano un genocidio se trata de derechos humanos

arratsalde on guztioi si hubieras nacido en distinta tierra

en otro país acaso vivieras y dirías sí en extraña lengua te habrías criado de otra manera ya fuera peor ya fuera más buena

vestidos tendrías de saco de seda zapatos de piel o alpargata vieja o irías desnudo perdido en la selva podrías leer cuentos y poemas

podrías podrías por todo esto piensa que importa tener las manos abiertas y acoger al que huye de sangrientas guerras

si hubieras nacido en aquella tierra podrías ser tuya la que es su tristeza

testigantza bat y hoy debatimos sobre moria y lo hacemos porque lo que pasa en moria es algo que legal y éticamente nos compete a todas las fuerzas presentes en esta cámara y debe hacerse desde una perspectiva de derechos humanos y de justicia social nos trae aquí la situación de emergencia humanitaria que desató el incendio en septiembre pero recordemos que las condiciones de hacinamiento e insalubridad que existían en el campamento ya tenían que habernos obligado a actuar con antelación

que el incendio en el campo de refugiados no era un accidente natural sino que era una de las posibilidades de las que venían alertando desde hace años y añadía lo que ha pasado no es solo por indiferencia sino también consecuencia de políticas activas del gobierno griego y las instituciones europeas que han provocado esta situación

pero hace tan solo unas semanas y en menos de un mes del incendio el nuevo campamento se ha visto azotado por inundaciones que han tenido que realojar en nuevas tiendas a las personas las organizaciones humanitarias europeas han denunciado en un manifiesto conjunto

está expuesto a los elementos y evoca la miseria

de recepción y de identificación de moria las decisiones políticas y los fracasos del gobierno griego y también de todos los gobiernos que conformamos la unión europea en este caso en moria deberían servirnos

una lección que está resultando a costa de muchísimo sufrimiento mientras sigamos abordando las crisis migratorias con enfoques seguritistas y no desde una perspectiva

vamos a ser cómplices de muchas morias y tenemos que dejar de ser cómplices tenemos que dejar de mirar hacia otro lado la situación migratoria

y debatimos en las instituciones públicas un cambio para el que la unión europea deje de ser la europa fortaleza y sea la europa de los pueblos porque hasta ahora

de abordar estas políticas desde una perspectiva de derechos y de salud pública la opción ha sido centrarse en la contención de los flujos migratorios

la detención de muchas de ellas en centros de internamiento y lo más grave muchas de ellas abandonándolas en el mar compartimos como se recogía en la iniciativa original

para establecer también las responsabilidades euskadi es un territorio que sabe lo que supone que su población tenga que huir para salvar la vida

y solidaridad avanzar en un camino que nos permita ser una sociedad que acoja a quienes ahora se ven forzadas a salir de su tierra en busca de una vida mejor

y me gustaría señalar lo que recogían periodistas desplazadas en moria

por que se escuchasen las voces de las personas refugiadas que estaban allí y no pasasen desapercibidas dentro de todo el caos que se formó decían las personas del campamento han visto confirmado su peor temor con las llamas pisándoles los talones con casos positivos de covid

la respuesta de la unión europea y del gobierno griego ha sido punitivista

porque no hay intención de dejarle salir de allí que lo que era una situación excepcional y transitoria se está consolidando como una nueva política migratoria y la situación va a peor

en el abandono de la población migrante en lesbos lo que está consiguiendo es quebrar a la población refugiada cuando violan sus derechos nos los quitan a todas urge que luchemos y apostemos por una europa diferente que no lo permita

y la salvaguarda de nuestra dignidad como sociedad

a las que quiero daros las gracias gracias por ser conforme al espíritu de la europa de los pueblos por demostrar que hay esfuerzos en marcha por crear una europa democrática e inclusiva que aprecia

nuestro reto es estar a la altura desde esta cámara a la solidaridad que representáis creemos que es necesaria

bajo los principios de la solidaridad real solidaridad entre estados solidaridad con las comunidades locales

en busca de refugio perseguidos por diversos motivos denunciamos que hay guerras que no se libran desde la industria armamentística sino que se utilizan otras armas como los impactos

y las políticas contrarias al desarrollo sostenible de todas las personas y ecosistemas por el contrario en lo que se insiste europa necesita personas migrantes para su sostenimiento lo hemos visto en la pandemia su fuerza de trabajo supone un elemento central de nuestras economías hemos alimentado

sin la que simplemente no sobreviviríamos sustentada sobre espaldas y cuerpos en su mayoría de mujeres migradas pero europa los necesitas sin derechos y por eso se han consolidado políticas que condenan a la población migrante de desprotección y contraria a los pactos internacionales necesitamos llegar a acuerdos que garanticen derechos para todas las personas que ya están en nuestro territorio

exprés de trabajadoras migrantes y aprobar regularizaciones por causas humanitarias como la que estamos viviendo eta hori hemen

y seamos coherentes en todas las instituciones insistimos que lo importante ahora es no dejar caer este acuerdo en saco roto ni que solo tenga importancia en la hemeroteca de esta cámara

para y también trabajamos para buscar y encontrar soluciones y mejoras aquí en euskadi por eso también queremos aprovechar

en elkarrekin podemos desde luego tenemos la voluntad de continuar avanzando en esta línea y con la mano tendida para el trabajo conjunto y el acuerdo es imprescindible impulsar políticas medidas y

en el que las extremas derechas están consiguiendo con sus mensajes degradar la calidad moral y ética de nuestras sociedades aprovechando que nos da miedo el mundo en que vivimos

izpiritua egokia izan dela en cualquier caso

quisiera debatir un poco con usted señor barrio porque me turba un poco su posición si quiere que le diga la verdad porque yo entiendo que usted viene e intenta pasar de perfil no he estado repasando las intervenciones de diciembre

proposición en la que se decían un montón de cosas y usted ha venido a hacer un poco lo mismo que hizo entonces pasa de puntillas sobre el debate de los puntos en cuestión que se están aprobando y usted nos remite a una especie de confianza

más oscuro porque ya me entran dudas con respecto a lo que haga la unión europea y como a la ley de la defensa y el compromiso con los derechos humanos

no había una dirección que crear entonces esa excusa no la tenía hoy tiene una buena excusa tiene la dirección

de cuestiones y yo creo que sería interesante porque

usted nos remite primero al marco europeo no evidentemente todos vamos a un marco europeo nosotros estamos dentro en europa no nos gusta nada la nueva propuesta de la comisión europea

otros derroteros de las cuestiones más complicadas y de aquellas cosas que

refugiadas que entendemos que básicamente son dos cuestiones uno es

no obliga a reubicar a todos los países de la unión europea una cantidad determinada un reparto solidario vamos a decir

esa obligación por digamos

de las personas a las que se quiere expulsar que es lo que está en el fondo del nuevo pacto

que el hecho de tener esa especie de ideal de unión europea respetuosa con los derechos humanos como una cosa que viene de lejos yo creo que a día de hoy casa poco con la realidad y nosotros le estamos hablando de pactos concretos que ha sellado la unión europea con terceros países el fondo fiduciario a través del cual ha externalizado las fronteras tenemos demasiados elementos a día de hoy sobre las políticas fallidas migratorias de la unión europea con resultado

catastrófico entendemos nosotros no le voy a decir que las políticas sean criminales directamente pero sí tienen un resultado criminal no y el hecho de que en el mediterráneo hayan muerto

yo creo que es una buena muestra de lo fallido de la posición de la unión europea

por qué tiene esa confianza no tenemos elementos no tenemos elementos para ello le voy a decir más

la sentencia de marzo del tribunal de estrasburgo

al estado español después de haberlo condenado a pagar indemnizaciones por devoluciones en caliente yo creo que es uno de los peores síntomas en los que europa bueno el tribunal de estrasburgo precisamente lo que hace es separarse ya directamente del convenio

o es una cuestión que crea jurisprudencia pero nos parece muy preocupante en cuanto a la deriva de las instituciones europeas en general entonces

esa posición no nos vale ese apoyo ingenuo de lo que puede hacer europa como a la ley de los derechos humanos yo creo que hay que exigir

repetir nuestra máxima solidaridad con quienes sufren con esos refugiados que tan mal lo están pasando

eh bildu precisamente el adalid de estas personas y de los derechos humanos nunca defendieron a quienes tuvieron que huir de su tierra de euskadi porque la banda terrorista eta les perseguía y asesinaba simplemente por no pensar como ellos

gracias presidenta y brevemente no no sé

en mi planteamiento y no es ingenuidad desde luego el planteamiento que yo le hago es un planteamiento

y con mucho convencimiento quizá el hecho de la confianza en la unión política de europa

mi principal compromiso político en términos de política

eso es un convencimiento no es ingenuidad es un convencimiento es un convencimiento basado también en los pasos

le he dicho antes que ahora se han reconocido los errores por parte del nuevo gobierno se han reconocido las insuficiencias se trata de crear un nuevo marco una nueva actuación en el tema

es complicado pero se están reconociendo errores y le vuelvo a decir europa sigue siendo la europa de la acogida

nuestros pueblos nuestras calles nuestras ciudades nuestras organizaciones a nuestros profesionales de todo tipo por nuestras calles con los que compartimos el día a día todos nosotros de sus distintos orígenes y procedencias no hay más que ver esa gran noticia

que algunos de ustedes se la quieren cargar por tantas críticas por tanta desconfianza y no es así los populismos los extremismos

y vuelvo a decir europa es un sueño para muchos lo sigue siendo con sus insuficiencias no hay más que pasar por nuestras calles por nuestras plazas por nuestros barrios
por nuestras organizaciones por nuestros partidos para darnos cuenta de que europa es acogida muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak bai zurea da hitza ez única y exclusivamente por cortesía parlamentaria para agradecer de nuevo
a elkarrekin podemos su apoyo a esta iniciativa presentada por eh bildu y reiterar el agradecimiento por su trabajo y por la gran labor que están haciendo a las asociaciones bueno a las organizaciones no gubernamentales que nos

no voy a entrar en ese intento de desvirtuar este acuerdo tan importante para nosotros

el todo es eta eskerrik asko

que las fuerzas políticas que defendemos la democracia y los derechos humanos enviemos un mensaje unánime claro y firme a toda la sociedad y en particular a quienes presentan a las personas migrantes como una amenaza

pues que las políticas de la unión europea no tenemos que dejarlas en manos que no sepamos que cada una tenemos en nuestra mano hacer las políticas que consideremos y luego me gustaría reconocer si hacemos un repaso a lo que fue la legislatura pasada

que en esta cámara se hayan llegado a muchísimos acuerdos y anteponer muchas veces pues nuestras ideologías

en favor de los derechos de las personas migradas y refugiadas y los hemos puesto sobre nuestras diferencias

se impulsaron por ejemplo ocho pnl de las que en siete de ellas

esto en mi opinión creo que merece también un reconocimiento y un reconocimiento sobre todo al esfuerzo de todos los grupos parlamentarios por alcanzar acuerdos

teníamos intención de pedir votación separada de algún punto y pedimos que el uno y el dos se voten separadamente
del tres cuatro y cinco uno y dos por un lado y el resto

komenigarria zela horrelako proposamena aurkeztea elaborar una estrategia vasca de reto demográfico

gobierno y lamentamos que el gobierno vasco hasta la fecha no haya cumplido uno de los compromisos que tenía adquiridos con la sociedad vasca la pasada legislatura este hecho es lo que ha motivado que la coalición partido popular ciudadanos haya presentado esta iniciativa instando al gobierno vasco a que elabore

edukitzeko lehenbailehen hemos logrado un acuerdo con los partidos que apoyan

su esfuerzo en lograr este acuerdo que creo que es un acuerdo bueno y satisfactorio para el conjunto de la sociedad vasca akordio batera heldu gara uste dut akordio ona dela eta

gobernuan dauden alderdiei por este acuerdo se insta al gobierno a elaborar una estrategia vasca

en el plazo de nueve meses esta estrategia será interdepartamental e interinstitucional y tendrá claramente un carácter transversal

buruzko estrategia bat egitea bederatzi hilabete epean como todos sabemos unas de las características de los países de nuestro entorno es la baja natalidad y los elevados índices de envejecimiento de la población que tenemos

estructural que tiene incidencia en múltiples materias como puede ser educación sanidad pensiones

sanitario los servicios sociales en definitiva tenemos una realidad muy preocupante que puede poner en riesgo incluso lo está poniendo ya el estado de bienestar tal y como lo conocemos uste dugu errealitatea guztiz kezkagarria dela eta

egon daitekeela no se trata de ser cata catastrofistas pero sí de describir

los datos así las proyecciones del eustat para los próximos diez años desde luego no nos llevan al optimismo sino a todo lo contrario

la tasa de crecimiento vegetativo seguirá siendo negativa el número de mujeres en edad fértil seguirá descendiendo así como el número de jóvenes

personas la población potencialmente activa en edad de trabajar entre los veinte y los sesenta y cuatro años perderá también

de más de sesenta y cinco años podría aumentar hasta en ciento cincuenta mil personas y su peso además correspondería con el

total la población en euskadi podemos decir también y concluir claramente que se ha estancado en los últimos ocho años y vemos también los datos

habitantes y en el año dos mil diecinueve son dos millónes ciento ochenta y uno mil novecientos diecinueve habitantes por lo tanto creemos

de la situación que actualmente tenemos en el país vasco de unos índices de natalidad muy bajos

autónomas sino con el resto de países de la unión europea y con unos índices de envejecimiento de población

también eso nos lleva a la conclusión de que también hay más

ámbito social y sobre todo que la tasa de reposición no se cubre

con la tasa de envejecimiento que como decía hemos llegado a un acuerdo sí que tengo también que señalar que ya la pasada legislatura tuvimos un debate sobre esta cuestión concretamente tuvimos en el año dos mil dieciocho un debate

cuestión específico sobre política familiar y el desafío demográfico y que muchas de las resoluciones también contempladas y aprobadas en este parlamento

a día de hoy no se han desarrollado por parte de este gobierno y señor urkullu aprovechando que está usted aquí pues esperemos que esta legislatura bueno pues se puedan

medidas que se aprobaron como digo en este pleno monográfico sobre política familiar y desafío demográfico por otra parte también creo que es importante tener en cuenta el ejemplo de la propia estrategia nacional elaborada por el comisionado del gobierno frente al reto demográfico que ya fue una institución organismo mejor dicho

del gobierno expresidente del gobierno mariano rajoy una estrategia también transversal y también con objetivos

importante y como digo que ha culminado también en una estrategia específica a nivel nacional

aprobamos un acuerdo importante yo sé que elaborar una estrategia sobre reto demográfico es una cuestión contemplada en el propio programa de gobierno pero también tenemos que decir que la pasada legislatura el propio lehendakari también adquirió

ocasiones y esa estrategia no llegó creemos que no se puede

en este sentido que contemple medidas a medio corto

que sea de carácter interdepartamental e interinstitucional y que contemple políticas que de modo transversal nos parece

tenga un diagnóstico certero de la situación contemple medidas que se vayan a implementar con la financiación correspondiente y espero también señor lehendakari que en ese sentido

presupuestos que se contemplen también plazos de ejecución y también evoluciones periódicas para que podamos conocer la implantación o mejor dicho la ejecución de las distintas medidas previstas sí que me ha parecido oportuno bueno pues que los grupos que apoyan al gobierno

del acuerdo hayamos podido incorporar un plazo de elaboración de esta estrategia de nueve meses teniendo en cuenta que hay que hacer un diagnóstico de la situación pero confiar

en este parlamento y sobre todo la sociedad vasca una estrategia específica sobre reto demográfico que como digo es una de las asignaturas pendientes de este gobierno y una de las cuestiones que demanda esta sociedad sin más demora besteriz gabe eskerrik asko

que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo el equivalente para lo que es la filosofía de andar por casa que menos hablar y más actuar

pero es difícil asumir riesgos y comprometerse en soluciones

porque mientras no garanticemos los derechos para todas las personas que deben interactuar para proyectar vidas dignas de ser vividas seguiremos sin ser lo suficientemente valientes como las circunstancias históricas requieren por un lado me gustaría partir de la base de que la mayoría de las fuerzas

de que euskadi se enfrenta en los próximos años al reto de adaptarse a retos globales al cambio climático a la crisis global de los cuidados al agotamiento

seguir basándose en un crecimiento económico ilimitado y además lo tenemos que hacer con el factor de una población cada vez más envejecida y las dificultades que todas las personas enfrentamos para llevar a cabo los proyectos de vida que deseamos porque el recorte de derechos que se propusieron como fórmulas para salir de la crisis de dos mil ocho no ha funcionado y ha impactado negativamente en la recuperación económica la brecha de la desigualdad se ha agrandado a costa de dejar a gente atrás lo dice el propio gobierno vasco en su encuesta sobre pobreza y desigualdad

por una transición ecológica que cuide el territorio en que vivimos y en el que también deben vivir las generaciones que nos sucederán gainera beti defendatu

gure familia kontzeptua honako hau baita como defendía nuestra compañera tinixara guanche durante la legislatura pasada en elkarrekin podemos cuando hablamos de familias

que deciden convivir o compartir la vida cotidiana que deciden cuidarse en las necesidades básicas pero también en las emocionales necesidades que se cubren en las materias más diversas educación salud principios cultura

personas que se acompañan en las alegrías y están para afrontar las penas y dificultades personas que están siendo el chaleco salvavidas de protección de un mundo socioeconómico que muy a menudo genera precariedad desigualdad injusticia personas que sostienen la vida que la han sostenido y siguen sosteniendo en medio de esta emergencia sanitaria especialmente

ese soporte que carga con un peso muy grande que carga con todas las tareas

para la reproducción social y el sostenimiento de la vida un grupo de personas que precisamente por ser el sostén de la vida son quienes van a sufrir y recoger

que ya se veía venir solo que ha reventado con la covid como de un sistema de protección y de empleo precario y que no está atendiendo a la realidad de una transformación demográfica en este país reto demográfico que es mencionado cada cierto tiempo por parte de las instituciones

pero no hay propuestas serias integrales concretas ni claras por parte de ninguna institución

y desde el punto de la ciudadanía y de los agentes que son motor y palanca para la consecución de los retos

son sobre todo fuente de confusión porque seguimos construyendo marcos teóricos buenísimos pero se quedan en eso en marcos teóricos

necesitamos poner la mirada en el largo plazo alinear políticas y esfuerzos

la coherencia de políticas pero también se necesita tener una visión estratégica para no dejarnos llevar por la agenda de las urgencias más inmediatas se necesita una coherencia de políticas se necesita poner en valor también el conocimiento social

si los instrumentos de los que nos estamos dotando están sirviendo para el propósito con el que se diseñaron se necesita ir de la mano

murrizketekin por eso vemos necesario que esta estrategia parta de la rendición de cuentas de los planes todavía vigentes y que no repitamos modus operandi de dejar las estrategias y planes en lo que parece ser a medio fuelle

no nos vamos a poner a construir otro marco teórico por eso nuestra propuesta de enmienda contiene unos puntos concretos para sortear las carencias que entendíamos se daban en la propuesta original creemos que estamos poniendo una mirada integral a este debate y sobre todo la exigencia

enfoques criminalizadores de la pobreza o que legitimen la idea de que no cabe la protección para todas las personas porque la economía no dará para proteger a todo el mundo esos enfoques son injustos e inmorales en muchos aspectos nuestra apuesta es una estrategia que revierta la proliferación de estos discursos

porque eso significa poner las vidas en el centro y la economía al servicio de la vida y no al revés une honetan erakusten dute halaber genero

en lo que están proponiendo que sea acuerdo de esta cámara que afrontemos un reto de país que debemos pensar conjuntamente sentándonos a esperar a que lleguen estrategias

creemos que el acuerdo de esta cámara debería ser más profundo y con mayor contenido lo que también nos preocupa de su acuerdo es que ustedes no suelen poner nada de lo que no estén haciendo ya

nada que ya esté mandatado por esta cámara ni nada a lo que ustedes no se hayan comprometido desde los planes que parece

y así estamos con algunos de los proyectos más legislativos esperados como es por ejemplo la ley de igualdad una cuestión sí compartimos con el grupo proponente y es que todo esto pasa

desde diferentes departamentos que faciliten coordinación de actuaciones y recursos en distintas instituciones pero que sean también innovadoras y transformadoras estrategias que aborden el reto demográfico en toda la complejidad y que vayan más allá de la actual dirección política pensada para familia

de un nuevo acuerdo que aborde el reto demográfico entonces no construyamos esa estrategia al margen de los pactos que nos están anunciando como país por la igualdad

no las construyamos al margen de los objetivos de país que la sociedad nos está demandando acordar guk familiak defendatzen jarraituko dugu

gorputzen erabilera planteatzen duen inongo politika babestuko y lo digo y espero que llegue y lo escuchen y lo reciban todos esos y loretas que también se sientan en este parlamento behitu miopia estrategikoaren ondorioak ditugu orain esku artean ez besterik

en el parlamento en la discusión sobre el reto demográfico de aquellos polvos estas tasas de natalidad si estas

en el dos mil dieciséis propuso entonces una estrategia interinstitucional permanente y de larga duración

y con gran torpeza en la puesta en escena llegó el pacto por las familias

nos dijo entonces que incrementar la natalidad era un objetivo de país itun honen bueltan burutu genuen hemen

egindako emendakinean ez da aipatu ere egiten y ahora nos proponen una

es como volver a empezar eta bilintxek bere bertsotan esaten zuen moduan

retos tienen más que ver con las políticas del buen vivir con establecer nuevos equilibrios con equilibrios más justos que

inguruan izandako jarrerarekin la verdad es que no hemos tenido ningún

simplemente se nos dijo que se estaba trabajando en una propuesta de transacción con el partido popular y que hoy a la mañana nos han confirmado que esa propuesta se había conseguido y que nos daban las gracias nos daban las gracias

presidenta el cambio demográfico es junto al cambio climático la transformación tecnológica y la recuperación de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia uno de los retos a los que se enfrenta la unión europea a

es por ello por lo que tiene una gran importancia situar el reto demográfico entre nuestras prioridades políticas

autonómico como nacional y europeo se da una combinación de diferentes factores el envejecimiento creciente de nuestra sociedad

que es consecuencia del éxito también de nuestro estado de bienestar pero se junta con la disminución de la tasa de natalidad el despoblamiento territorial

migratorios lo que supone un desafío para la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y que puede poner en riesgo la cohesión social la vertebración territorial y nuestro modelo de convivencia este cambio demográfico afecta tanto al ámbito de la salud

las pensiones al crecimiento económico la sostenibilidad del gasto público a la solidaridad intergeneracional y a la composición

el efecto de la crisis económica el empleo la temporalidad la precariedad laboral la reducción salarial sufrida en los últimos

el retraso de la emancipación de los jóvenes los cuales retrasan la decisión de

disminuyendo de esta forma también el número de nacimientos y en todo ello debemos de tener en cuenta las necesidades diferenciadas o realidades diferenciadas

es por ello que tiene una gran importancia incluir la perspectiva de género y la igualdad entre

en el mismo es importante contar con un buen diagnóstico de la situación actual

las medidas que se quieran adoptar la financiación con la que se cuente en los presupuestos y los plazos de ejecución de estas y tiene especial importancia

que se haya considerado que se deben poner en marcha y como es un reto que afecta a las diferentes

es importante la coordinación y la colaboración a los distintos niveles europeo estatal nacional autonómico y local dentro del consejo

demográfico esta estrategia tiene que tener un carácter global y transversal dado que tiene un carácter interdepartamental que diseña una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática

poblacional del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante esta estrategia tiene como objetivo fundamental

de derechos a la ciudadanía en todo el territorio mediante

las administraciones y el aprovechamiento de los recursos porque para abordar el reto demográfico hay que garantizar la igualdad de derechos de oportunidades y de libertad de elegir vivan donde quieran es necesario cambiar nuestro modelo productivo y hacer una transformación ecológica de nuestra economía y combatir la brecha de desigualdad y de la pobreza teniendo como principio indispensable la cohesión social y territorial y todo ello sobre la base del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible

de la agenda dos mil treinta y esta estrategia general se ha de elaborar con la colaboración y la cooperación de las comunidades autónomas y entidades locales

y es por ello por lo que en el acuerdo de gobierno se recogen medidas dirigidas a ello tanto en el ámbito de los mayores como respecto a los jóvenes respecto a la familia e infancia respecto a la migración y contra el despoblamiento rural

común y coordinada con el objetivo de ofrecer a la juventud vasca una acción transversal que facilite su emancipación y pueda desarrollar

proyecto de vida en la iniciativa que hoy debatimos hemos conseguido una enmienda transaccional con el grupo popular ciudadanos y le agradezco

al grupo popular a la señora garrido su colaboración para poder haber llegado y conseguir el acuerdo que hoy hemos firmado y que creo que recoge cosas importantes y donde se recoge el compromiso

en la colaboración con el resto de instituciones en el desarrollo de esas políticas de fomento de la natalidad de ayudas a la conciliación laboral y familiar

la lucha contra el despoblamiento rural entre otras que como he señalado en mi discurso son importantes y además elaborar

y establece también un plazo para el cumplimiento y son

no estábamos de acuerdo con el planteamiento del grupo eh bildu que consideraba necesario la creación en el parlamento vasco

ponencia para reflexionar sobre los cambios demográficos o tener la estrategia interinstitucional lista en tres meses porque si queremos

que además por parte del grupo eh bildu se solicita continuamente evidentemente en el plazo de tres meses es muy complicado

la estrategia el plan etcétera es mucho más

mucho más lógico el plazo que se plantea en la enmienda transaccional que nosotros hemos firmado hoy por lo que respecta al grupo elkarrekin podemos sigue hablando de la necesidad de dar participación

y nosotros ya les señalamos dentro del pleno de uno de octubre cuando

que esa participación ya se va a producir se va a producir y se está produciendo dentro de la elaboración de la estrategia para personas cuidadoras no profesionales y contemplaba el análisis de esa situación las medidas a adoptar la cronología de actuación y el presupuesto necesario

necesario lo que planteaban ustedes una de las cuestiones que también planteaban era la necesidad de realizar ese informe diagnóstico

lo recogemos de una en cierta forma dentro de nuestra enmienda y luego

hablábamos de plasmarlo dentro de un plan y establecíamos ese plazo de nueve meses creo que

desde luego el planteamiento de nuestra enmienda transaccional y por tanto

el objetivo de empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo

este significado no puede reflejar mejor cuál es la actitud del gobierno vasco con respecto a esta materia tiene un objetivo bien

ese objetivo es difícil y esa dificultad que entraña el objetivo es la que supone un desafío para la labor de la administración y este estímulo es el que ha hecho que el gobierno vasco incluyera en el programa de gobierno

la elaboración de un plan para dar respuesta al reto demográfico se propone que esa respuesta sea en coordinación con el resto de instituciones con los departamentos y que se haga sin perder el contacto con la sociedad civil erronka demografikoari buruz

las personas mayores de cien años son el doble que hace una década non dago hor berri txarra euskadin pertsonak

izango ez bagenu otro factor importante es el de la natalidad

un diez por ciento en este sentido considero que es importante remarcar que existen dos variables cuando hablamos de la natalidad una variable es la cultural

a la voluntad de las familias a tener hijos o hijas y otra vertiente es a la que podríamos llamar la vertiente económica que es la que analiza la capacidad o la posibilidad que tienen esas familias cuando quieren tener hijos o hijas con respecto a la primera

la que analiza la voluntad de las familias creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos como se ha dicho yo creo que ni siquiera por cuestiones demográficas o de sostenimiento del sistema de bienestar incluso del sistema de pensiones las administraciones pueden tener esa tentación

creo que hemos superado afortunadamente un escenario en el que se imponía un único modelo de familia y en el que se juzgaba a las personas especialmente a las mujeres

no tener hijos o hijas la sociedad ha evolucionado y creo que eso es algo

sí que es cierto que existe esa otra vertiente y que es la que debe preocupar y ocupar especialmente a la administración esa vertiente que se basa en generar esas condiciones necesarias para que las personas no se vean forzadas o impedidas muchas veces muy dificultadas

querrían tener en este sentido el gobierno vasco viene aplicando medidas muy concretas para ayudar a evitar esas barreras que a veces se pueden encontrar esas familias medidas la mayoría de ellas que se contemplan en marco del plan institucional de apoyo a las familias del año dos mil dieciocho medidas concretas se ha aumentado la ayuda por segundo hijo de dos a tres años medidas concretas se han equiparado los permisos de ambos progenitores medidas concretas ha aumentado en cuatro semanas el derecho a la excedencia de las familias monoparentales medidas concretas en breve se aprobará ya se ha anunciado el incremento de las ayudas para la contratación de cuidadores

una cosa que se venía reclamando por parte de las asociaciones de familias y que se va a hacer no solo se va a aprobar sino que se va a hacer con efecto retroactivo desde el uno de septiembre del año dos mil veinte

por si esto no fuera suficiente existe una segunda razón que avala que euskadi debe tener una actitud abierta y acogedora con respecto a la inmigración

también por una razón meramente económica no podemos obviar que esas personas migrantes ayudan al aumento de la recaudación tanto directa como indirecta contribuyen al sostenimiento de la seguridad social e impulsan el consumo entre otras muchas razones además

fundamental de cara a mantener el sistema de bienestar tal y como lo concebimos aumentando el saldo de población en definitiva

que el reto al que nos enfrentamos es un reto común en el conjunto de países de la unión europea en euskadi nos afectan los mismos problemas que afectan al resto de países de la unión

aunque no lo hacen de la misma manera ni nos afectan en el mismo grado y así como nos afecta a nosotros afecta también al estado

es importante la colaboración interinstitucional en el estado nos alegra ver que en el estado se está trabajando también en este sentido y se ha puesto en marcha

el gobierno vasco ha participado en esta comisión realizando propuestas y poniendo de manifiesto que necesitamos una financiación acorde a la magnitud del reto

es cierto como he dicho antes que los problemas nos afectan de igual manera y así como en el listado se están centrando especialmente

en euskadi nos vemos mucho más afectados como se ha dicho anteriormente por un bajo índice de natalidad

que hay algunas comarcas especialmente puede ser mendialdea en araba que se ve afectada por el despoblamiento rural y el gobierno vasco de la mano de la diputación foral de álava también está trabajando para ponerle

son las razones por las que nosotros presentamos nuestra enmienda y por la que hemos acordado con la señora garrido del partido popular

una enmienda transaccional y desde aquí quiero agradecer tanto a la señora garrido

la disposición que han tenido para llegar a un acuerdo también quiero agradecer

batetik a la señora gonzález decirle que obviamente nosotros entendemos

que no se podía demorar obviamente está contemplado en el programa de gobierno pero yo creo que no está de más

no cumple los compromisos adquiridos pues no está de más espolear

adquiridos en esta cámara como decía también los compromisos que el propio gobierno adquiere y adquiría además en esta materia desde la pasada legislatura además creo que el propio lehendakari

referencia en múltiples ocasiones y creo que es una cuestión que debe y esperemos que así sea estar en la agenda de este gobierno de forma absolutamente prioritaria a la señora kortajarena esan nahi diot bueno claro es un tema recurrente también usted aquí trae en muchas ocasiones temas repetitivos cuando

un pequeño tirón de orejas quiero recordarle que soy mujer señora kortajarena y que

hemos compartido debates en esta cámara hemos llegado a muchos acuerdos también muchos de ellos además por unanimidad afortunadamente que tienen que ver con la mujer

no dudo de su preocupación por las cuestiones que atañen a la mujer y tampoco espero que usted dude de mi preocupación en este sentido bueno porque ahí están también mis iniciativas y en los múltiples debates

de estos años como parlamentaria en relación a su iniciativa y por responderle bueno nosotros entendemos que en estos momentos constituir una ponencia demoraría la aprobación mejor dicho la elaboración de esta estrategia para su remisión al parlamento vasco en su caso ya se pone un plazo creo que al margen de que

de la situación pero un análisis previo para la adopción de esas medidas que deben acudir acompañadas de una consignación presupuestaria de un plazo de ejecución creo que hay muchos

y por lo tanto creo que lo que correspondía en este momento es pedir ya esa estrategia

que adquiere nuevamente este compromiso y esperamos por lo menos vamos a dar un voto de confianza esta vez que esta vez pues sí cumpla besterik gabe eskerrik asko

en la enmienda presentada venimos yo creo mostrando coherencia en todo lo que hemos defendido lo defendido sobre este tema en la legislatura pasada y también los peros señalados cuando

señora garrido nosotras seguimos con la mano tendida para alcanzar acuerdos comunes pero insistimos en que sean acuerdos englobados en la justicia social en el cambio

cada vez más obstáculos para sobrevivir y no digamos ya para vivir de manera feliz así que bueno creo que

viendo de dónde partían las propuestas de las enmiendas recibidas nos preocupa de la enmienda transaccional propuesta que un poco el compromiso se arranca a seguir como estamos

o a los que nos piden paciencia para hacer su seguimiento y paciencia para ver su recorrido y así estamos con algunos eso como decía antes

y bueno no entendemos además que se constate que haya planes y estrategias a las que no se dé recorrido que estamos necesitamos subir

si vamos a seguir sin poner en valor lo que nos une más

y cuántos marcos teóricos son necesarios abrir sin entrar y sin bajar a la tierra bueno igualmente vamos a seguir aquí con la mano tendida para alcanzar acuerdos que

consensuada y refuerzan el mensaje como clase política pues mejor que mejor eskerrik asko

se podían haber discutido como se hace en otras ocasiones pero no se ha dado el caso

usted decía medidas concretas no hombre si las medidas concretas

son las políticas de conciliación que incluso que incluso en unas jornadas organizadas en el marco del pacto por las familias por la señora artolazabal ya se demostraron digamos bastante inútiles en ese sentido pues venga dios y lo vea

y en cuanto a medidas concretas que se nos hable de una medida para responder a las necesidades de conciliación que se da ahora en las familias

por no hablar de muchas discusiones que hemos tenido en torno a esas ayudas a la conciliación

que precisamente no están adaptadas y son inaccesibles para todas esas personas que tienen mayores dificultades para iniciar un proyecto familiar o no en el que se quiera tener hijos eta guk ez dugu konpartitzen hemen herri helburua natalitatea igotzea denik nosotros entendemos que tenemos un reto que va mucho más allá que eso

nuevos equilibrios entre el trabajo productivo y reproductivo tiene que ver con los cuidados con la distribución y la redistribución de la riqueza con el empleo de calidad

euskal sozialistak sánchez andrea bertatik sí desde el escaño porque voy a

señora gonzález nosotros no es que bajemos

tierra continuamente cuando elaboramos nuestras políticas es que parece que

aceptamos o llegamos a un acuerdo con ustedes está estupendamente lo que salga de ahí y cuando no aceptamos o no acordamos parece que solo lo que usted planteaba era lo más importante del mundo y si no se acepta eso es que no es bueno lo que

y si elaboramos o recogemos el compromiso concreto de hacer el plan y ponerle un plazo está mal pero si no lo metemos también está mal claro solo si ustedes intervienen en ese acuerdo pues la solución a lo mejor les parece buena y no es así yo creo que

la enmienda transaccional recoge un acuerdo concreto de elaboración de ese plan marca un plazo para esa elaboración

y eso es lo que hay que ver ya he indicado por qué no estábamos de acuerdo

que usted ha planteado otras están recogidas dentro de nuestra propia enmienda transaccional que usted planteaba con lo cual con esas al menos debería de estar

un plazo real un plazo que puede ser un tiempo de nueve meses un plazo real para poder llegar dar esa participación necesaria que se hace por parte del gobierno vasco cuando se lleva a cabo y se elaboran estas estrategias para luego elaborar los planes y eso es así

el de tres meses que ustedes planteaban porque es que eso no es real es que en tres meses no da tiempo a poder realizar bien si se quiere realizar

trabajo y por tanto por eso hemos llegado al acuerdo de esa enmienda transaccional tal cual la hemos firmado y por mi parte nada más y muchas gracias

bueno hemos alcanzado un acuerdo que fijaba el gobierno un plazo de nueve meses

nueve meses para que pueda gestar un plan que estudie bien la situación bueno centrándonos en las cosas concretas

señora gonzález nos ha hablado de marcos teóricos y ha empezado usted citando a marx

ha sido usted y por otro lado me gustaría decirle una cosa mire

de la pena que le da no ser capaz de llegar a acuerdos de la autocrítica que tenemos que hacer todos de lo triste que está aquí porque no somos capaces de llegar a acuerdos y en buena parte puedo compartir con usted

cuento mal son treinta y uno más diez cuarenta y uno más seis cuarenta y siete y ha habido un acuerdo de algunos grupos que hemos llegado y vosotros no habéis llegado a un acuerdo hemos ido a hablar con vosotros a ver si os queríais sumar tampoco nos habéis hecho ninguna contrapropuesta por lo tanto acuerdo ha habido otra

atera duzun hori y luego habla usted de una medida concreta que se va a empezar a aplicar

es que tomen medidas para solucionar los problemas que van surgiendo y ahora nos ha surgido un problema

los tiempos son los que son pero se aplica con carácter retroactivo

a solucionar el reto demográfico no sé si nuestra enmienda ayudará o no lo que me gustaría saber es